un problema de orden público zirela esan zuen

gracias presidenta buenas tardes creo que voy a ser bastante breve

eh bildu una iniciativa que nosotros pensábamos que incluso podía retirarse podía llegar a retirarse finalmente la mantienen

variados algunos recurrentes y de ahí nuestra enmienda de totalidad que efectivamente podía haber sido esa podía haber sido otra

ninguna finalmente nosotros presentamos esa enmienda de totalidad en todo caso ya digo los representantes de eh bildu vienen aquí a tratar de convertirse en adalides de la defensa de determinados derechos

hablan de los derechos laborales y hablan de los derechos sociales y nosotros no admitimos que ehb nos dé lecciones al resto sobre la defensa

de credibilidad ustedes no pueden hablar de derecho a la huelga de derechos laborales y de derechos sociales cuando hay que recordarlo que ustedes siguen sin condenar las vulneraciones producidas

que ustedes vengan a hablar de derechos laborales sociales de derecho a la huelga

no lo admitimos por otro lado en su segundo punto hablan de solidaridad y apoyo a esas dieciocho personas juzgadas según el grupo

sus derechos laborales tenemos que decir claramente que esto es esto es una falsedad evidente estas personas no fueron detenidas ni juzgadas por defender sus derechos laborales sino por supuestamente presionar a otros ciudadanos es decir pretender vulnerar los derechos de otros ciudadanos y tratar de impedir su ejercicio del derecho al trabajo

o retener a un trabajador que pretendía ejercer su derecho al trabajo por lo tanto no fueron juzgadas por defender sus derechos laborales

determinadas actuaciones en contra de la ley lo que no está claro aquí es exactamente qué plantea ehb si que está bien pinchar las ruedas de un trabajador que pretenden ir al trabajo o que no fueron ellos los autores de estos actos quizás sería interesante

la sensación de que ellos están a favor de que se cometan ese tipo de actos para supuestamente defender no sé qué derechos y finalmente hablan de que se oponen a los recortes sociales del gobierno central e insta al gobierno vasco a no aplicar

vienen a plantear algo así como que el gobierno vasco cometa una serie de

hemos presentado una enmienda de totalidad en la que manifestamos nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en particular

de dos mil once y lógicamente

respetamos las decisiones de la justicia y nos ratificamos nuevamente en ese respeto por las decisiones que adopta en todo caso también la enmienda de totalidad planteada por el grupo nacionalista vasco nos parece

en su segundo punto si bien rechaza los recortes laborales y sociales del gobierno de españa cosa que compartimos vienen algo así a contraponer esos recortes

entonces es cuando vuelve a tocar que recordemos que también desde el autogobierno se puede recortar es decir no es contrapuesto y efectivamente

recortes sociales por lo tanto lo más importante no es la defensa del autogobierno sino sobre todo qué se hace y cómo se utiliza ese autogobierno por eso

enmienda de totalidad y decir claramente que upyd está a favor del derecho a la huelga

se opone a los recortes laborales y sociales del gobierno de españa actual y del anterior nos opusimos a las diferentes reformas laborales que hubo en fin

debatimos continuamente en este parlamento en todo caso votaremos en contra de esta iniciativa votaremos a favor de la enmienda de totalidad

de la enmienda del grupo nacionalistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna

nola ez hurbiltasun eta arintasunean y en este sentido y como exponente de la defensa de nuestro autogobierno siendo el concierto económico uno de los pilares del mismo

en la permanente actualización y adecuación del concierto económico es más

animamos al consejero a que así lo haga porque de esa actualización depende que contemos con más recursos que

asimismo el gobierno ha mostrado su firme voluntad de defender y mantener el modelo vasco de bienestar que se concreta en la defensa de las políticas sociales como son la educación la sanidad y la lucha contra la exclusión social si bien es cierto que la menor recaudación obligará

programas o servicios que no son básicos pero garantizando en todo caso los contenidos esenciales de la educación la sanidad y se mantendrán

social como intuyo que este reconocimiento de que el gobierno tendrá que ajustar el gasto y

intuyo que algún portavoz le entren ganas de decirnos que hemos empezado a enseñar la patita únicamente decirles que lance la primera piedra aquel que esté libre de hacer ajustes en el presupuesto que esté

y junto con lo anterior el gobierno además está preocupado y además de estar preocupado está ocupado que es lo importante en dar respuesta

es decir el empleo ayer mismo el señor aburto en sede parlamentaria nos dio cumplida información de las medidas que en materia de empleo adoptará el departamento a corto medio y a largo plazo y además en breve presentará un plan

dar impulso al emprendizaje y a la creación de puestos de trabajo para jóvenes lo cierto es que los datos no invitan al optimismo

al corto se refiere y sin duda uno de los grandes retos del gobierno vasco es

para crear puestos de empleo y nosotros animamos

animamos al gobierno a que así sea a que trabaje por incentivar nuestra economía para generar puestos de trabajo eskerrik asko

bien en el primer punto de la iniciativa original que se trae a esta cámara pide que manifieste este parlamento que el derecho de huelga es un derecho fundamental de todo ciudadano también en la enmienda presentada por el partido nacionalista vasco se habla de la huelga como derecho fundamental de los trabajadores y como instrumento para la defensa y reivindicación de los derechos laborales y sociales bien pues vamos a hablar del derecho a la huelga y vamos a hablar de la génesis de este derecho

tiene antecedentes mucho más antiguos tenemos que remontarnos

al valle de los reyes para ya empezar a hablar de huelga se da fundamentalmente en la revolución industrial cuando este derecho

y la ciudad de chicago es un referente inevitable cuando hablamos de esta

y de ahí viene la conmemoración del uno de mayo también en españa es antigua es antigua la existencia de las huelgas

y lo que es evidente es que el formato de huelga ha ido sufriendo un proceso evolutivo paulatino pasando de ser un instrumento de reivindicación y de protesta para conseguir unas mejoras en las condiciones laborales a las huelgas políticas que se han ido desarrollando durante el pasado y el presente siglo

público instituido y quiero decir aquí que se ha dicho que las huelgas no se hacen porque uno se aburra pero no solamente se hacen para defender

sindicales nacionalistas hicieron al gobierno del señor lópez nada más entrar y ahí todavía vulneraciones de derechos

desde el punto de vista jurídico a nivel internacional el derecho de huelga encuentra cobertura en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo

y en lo referente a nuestro país esta materia jurídica presenta una cierta particularidad y lo décimos porque a pesar de que la constitución integra el derecho a la huelga no ha sido objeto del correspondiente desarrollo legal la constitución es cierto como decía en su artículo veintiocho

reconoce el derecho a la huelga como un derecho fundamental e indica que se reconocen

las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad porque este derecho fundamental no nace de una manifestación de este parlamento

sino nace de la consagración constitucional pero el desarrollo de este precepto

debiera haberse producido por ley orgánica y esta ley sin embargo después de más de treinta años de vigencia de la carta magna no ha llegado a dictarse siendo quizás la última gran ley constitucional pendiente por tanto el derecho de huelga se encuentra regulado en una norma preconstitucional como es el real decreto ley de relaciones de trabajo del setenta y siete

tal peculiaridad normativa sin duda prolongada más allá de lo inicialmente previsto ha conducido en muchas ocasiones a una

en muchos casos ha dado lugar a una cierta litigiosidad que pone de manifiesto la necesidad de crear una nueva normativa que regule el ejercicio de este derecho

colectivo que requiere la participación colectiva ya que en caso contrario estaríamos ante un simple incumplimiento contractual pero no podemos negar por mucho que aquí se ha querido hacer la evidencia de que este derecho fundamental en muchas ocasiones colisiona con el derecho al trabajo derecho

derecho reconocido en nuestra carta magna en el artículo treinta y cinco pero a pesar de este reconocimiento constitucional de forma sistemática en las jornadas de huelga

que es necesario conciliar para que el ejercicio de ambos se pueda ejercitar con arreglo a la decisión

lamentablemente la realidad es bien distinta y en la mayor parte de los casos

todos somos perfectamente conocedores de que cada jornada de huelga viene acompañada de presiones de coacciones de amenazas por parte de lo que se viene a llamar como piquetes informativos que

o represivos los cortes de carreteras las concentraciones en las entradas de las empresas con el fin de presionar y coaccionar a los trabajadores

deciden acudir a su centro de trabajo las visitas puerta a puerta a los numerosos comercios invitándoles utilizando un eufemismo

las pérdidas que ello les ocasionaran o si quieren o no cerrar son actitudes reiteradas que se han convertido en un comportamiento y un modo de hacer estructural de los huelguistas y no nos vale

propios de grupos incontrolados porque todos somos conscientes de que en muchas ocasiones este tipo de actitudes responden a comportamientos inducidos planificados

al fracaso por parte de sus promotores que con este tipo de actitudes no hacen sino viciar desnaturalizar y desprestigiar la esencia de este derecho fundamental el ejercicio del derecho a la huelga debe ser sustentado en una actitud proactiva pero voluntaria en un comportamiento reivindicativo pero potestativo y en una disposición que tenga como derecho fundamental la libertad de elección

atentar contra otro derecho fundamental como es el deseo de poder desarrollar y desempeñar libremente

el grupo proponente sabe bastante poco el derecho a la huelga no puede convertirse en un supuesto obligatorio y el ejercicio de la huelga como recurso de protesta no puede transformarse en

no respetando los servicios mínimos establecidos y tomando como rehenes a los propios ciudadanos y la prestación y el mantenimiento de unos mínimos servicios públicos debe ser una cuestión prioritaria para los poderes públicos y no quiero irme sin terminar a pesar la gracia que parece que le provoca mis palabras sin referirme al proponente

porque llama la atención una vez más señores de bildu que quien todavía no ha condenado los ataques contra el primer derecho fundamental de toda persona se erijan en recalcitrantes defensores de otros derechos fundamentales

a un nuevo capítulo más de la hipocresía de bildu en toda su extensión y en todas sus peticiones y por empezar por la última por la de los recortes deberían de aplicar lo que ustedes aquí plantean en aquellas instituciones en las que gobierna

un claro ejemplo de la manipulación que de los hechos y del lenguaje suele hacer el mundo de bildu resulta cuando menos curioso el título de la iniciativa

con semejante título debiera ser merecedor de una votación afirmativa sin más discusión

y nadie puede ser detenido por el ejercicio de un derecho fundamental siguiendo con la manipulación del lenguaje habla de que son juzgadas por defender sus derechos laborales

es que no han sido juzgados por eso no han sido juzgados por defender sus derechos laborales han sido juzgados en aplicación del artículo trescientos quince punto tres del código penal

finalmente han sido absueltos y si se ha producido un exceso ustedes deben ir a los órganos respectivos donde se debaten estos excesos no traerlos a esta cámara si es que ha habido un exceso pero ya le digo si ha habido un procesamiento cuando hay un procesamiento y una imputación

de indicios son juzgadas como le decía por conductas presuntamente delictivas pero desde bildu con iniciativas como estas y tantas otras

que en todos los encausamientos que todos los juicios son arbitrarios e injustos siempre

del derecho fundamental a movilizarse que no sabemos muy bien ese derecho fundamental a movilizarse dónde está consagrado

aunque muchos ya conocemos cuál han sido esos medios de movilización que ha utilizado bildu en muchas ocasiones todos somos conscientes del formato de huelga que defiende bildu que no es otro que el de la huelga impuesta con diferentes intensidades de violencia pero sobre todo de obligado cumplimiento para el conjunto de la ciudadanía

ha sido el comportamiento de lab primo sindical de bildu cuyas jornadas de huelga se sustentan en sabotajes amenazas coacciones y en más de una ocasión agresiones

libremente eso sí a las movilizaciones y huelgas con envíos

de cartas y panfletos pues desde el partido popular no apostamos por este tipo de huelga apostamos por un derecho de huelga basado en el respeto

un modelo que respete el derecho al trabajo y un modelo que preserva el mantenimiento de los servicios públicos básicos para el conjunto de la ciudadanía apostamos por conciliar

y defendemos que si se producen conductas delictivas durante las movilizaciones laborales

las fuerzas de seguridad y actúe la justicia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

arratsalde on guztioi yo también voy a empezar a hablar del derecho de huelga pero la verdad es que la intervención la última parte de la intervención de la señora otadui

eso de ponerse la tirita antes de la herida y quiero hacer algún comentario porque nos dice la señora otadui aquí quién está libre de hacer

algunos portavoces criticarán que mi gobierno tiene que hacer recortes el señor gatzagaetxebarria

que vamos a pedir una revisión del concierto

esto es ponerse la tirita antes de la herida y sobre todo es pasar la pelota a otro es decir

la negociación del convenio cosa que no es una cuestión particular de este gobierno vasco

porque el concierto ustedes lo tienen que negociar con el gobierno de madrid y claro

le diría a su gobierno al gobierno del partido nacionalista es que antes de poner deberes al resto hagan los suyos el señor gatzagaetxebarria que nos traiga aquí un buen presupuesto y ya hablaremos

se lo digo con toda vistosidad me ha sonado a ponerse la tirita antes de la herida pero bien

es cierto bueno los socialistas consideramos como aquí ha dicho reiteradamente

es un derecho fundamental de los trabajadores y ha sido una herramienta fundamental y no voy a hacer ninguna digresión histórica en este momento como ya se ha dicho aquí sobre la importancia que ha tenido el derecho de huelga

conseguir importantes reivindicaciones de los trabajadores de la clase trabajadora bien pero el derecho de huelga en ningún momento entendemos los socialistas se puede contraponer o puede ser algo que anule el derecho al trabajo y digo que no anule el derecho al trabajo incluso en el momento

esté ejercido se está ejerciendo por parte de la clase trabajadora

es un límite básico y además creemos que el derecho a la huelga en ningún caso en ningún caso debe ser sinónimo de extorsión y no puede ser sinónimo tampoco de imposibilidad de la libre circulación de las personas

que también hay que preservar incluso cuando se ejerce un derecho fundamental como es el derecho a la huelga

sobre la situación económica y lo que está ocurriendo y no nos duelen prendas efectivamente y además nos oponemos los socialistas estamos radicalmente opuestos

las consecuciones de los trabajadores y de la sociedad durante muchísimos años recortes sociales y laborales limitación de derechos individuales

y privatizaciones que benefician a los amigos de gobiernos de la derecha se están produciendo

que nos afecta de una manera muy rotunda pues efectivamente los socialistas

a esta situación por lo tanto también apoyamos diferentes formas de movilización contra esto y las hemos apoyado y las vamos a seguir apoyando a estos recortes y a la ofensiva global que se está haciendo nosotros

y estamos también apoyando huelgas y consideramos que la huelga es una herramienta es un recurso legítimo por quienes tenemos que defender todas estas consecuciones que tanto nos han costado y que nos están recortando y que nos están

de quitar pero todo esto como decía anteriormente señora ugarteburu tiene un límite todas las movilizaciones tienen un límite y es el no transgredir la libertad y los derechos de otras personas de otros ciudadanos y de otras ciudadanas no se puede nosotros situamos una línea roja la línea roja que situamos los socialistas en las movilizaciones que deben ser rotunda y que deben ser claras está en el respeto

que no quieren movilizarse o que incluso quieren trabajar ese día y esa es una línea roja que no se debería traspasar como digo

movilizaciones que acaben en enfrentamientos que sean

ni acciones que limiten los derechos de las personas porque cuando esto ocurre cuando esto ocurre

tres patas tiene tres elementos y el primer elemento que suele funcionar cuando hay una trasgresión

o cuando se trasgrede el derecho a la libertad de otras

tiene que actuar y en primera instancia actúa el ejecutivo efectivamente

efectivamente qué hizo en ese momento el ejecutivo qué hizo la policía democrática integral de este país

en un suceso que es impedir la libre circulación de otras personas cómo impidieron esa libre circulación de esa persona

lo que ya impidió a alguien que estaba ejerciendo su derecho

se le impidió que siguiera ejerciendo ese derecho y entonces actuó el estado de derecho como le decía y actuó mediante la ertzaintza identificado a esas personas

lo que hizo fue pues abrir el atestado correspondiente que a dónde llega al fiscal y aquí entra otra de las patas del estado de derecho

a las tres y entonces actúa el sistema judicial y le voy a decir nosotros los socialistas tenemos por costumbre

porque como por encima de todo respetamos el estado de derecho y respetamos la división de poderes y consideramos que el poder judicial es básico para que podamos mantener el estado de derecho de libertad y de democracia que tenemos aquí por eso

yo no voy a valorar aquí si producto del pinchazo de tres ruedas a un vehículo

derecho de esa persona que estaba ejerciendo su derecho al trabajo y de imposibilitárselo

muchas o pocas son interpretaciones que el poder judicial en virtud de su independencia

las toma y toma esa decisión esa petición que además como usted ya ha comentado y se ha comentado aquí anteriormente pues ha quedado en agua de borrajas porque al final ha habido una sentencia absolutoria

si seguimos discutiendo de esto a discutir del sexo de los ángeles o de cualquier otra cosa estamos discutiendo es que el fiscal se pasó bueno pues mire usted es una interpretación

hizo lo que tenía que hacer otra cosa es que el juez

que no pues que haya que absolver a esto bien dicho esto nosotros

que se ajusta a lo que entendemos que

subyace en este debate subyace que defendemos el derecho a la huelga

defendemos como no podía ser menos la defensa del autogobierno en contra de los yo a pesar de que el señor maneiro decía de que en esa parte de su enmienda parece que se contraponen pues no yo creo que como se demostró

actuó iban íntimamente ligados la defensa del estado de bienestar la oposición a los recortes con la defensa del autogobierno lo hemos demostrado

insisto por el gobierno del lehendakari patxi lópez y por lo tanto nosotros

esa enmienda que usted ha planteado porque la consideramos que resume perfectamente un poco la situación

gracias de nuevo señora presidenta bien es que se hacen una serie de afirmaciones

que menos mal que una está aquí y las ha hecho porque claro si ustedes sacan luego las afirmaciones de aquí

yo no he criminalizado las huelgas en absoluto ni el derecho a la huelga y si desde luego cualquiera que lea mi intervención que no sean ustedes

no saca esa conclusión en absoluto pero hay una realidad

quien quiso hacer huelga pudo hacer huelga no todo el que quiso trabajar pudo trabajar porque ustedes lo han dicho aquí

y le pincharon las ruedas esa persona iba a trabajar pudo finalmente ejercitar su derecho a trabajar no

ustedes de qué clase de huelga me están hablando yo comprendo perfectamente

muy enfadada nosotros somos los primeros que lo hemos dicho nosotros lo comprendemos

de que quien quiera hacer huelga como protesta

pueda hacerlo pero tiene la libertad para hacer huelga él no para obligar al de enfrente

que las huelgas son obligatorias se lo he dicho ese es el concepto que tiene bildu de la huelga es

cuando ustedes convocan una huelga cuando el sindicato lab convoca una huelga es obligatoria

ya se lo he dicho los derechos son fundamentales para ustedes algunos verdad otros no

fundamentales sus derechos los de los demás amigo esos tampoco

que cuando se convoca la huelga el derecho al trabajo no existe el derecho de quien quiere trabajar no lo tiene reconocido

obligatoria y si décimos que hay que compatibilizar el derecho de huelga

estoy criminalizando el derecho a la huelga y estoy criminalizando las huelgas y las movilizaciones

y que siguen teniendo siguen utilizando el mismo lenguaje

en todo y ustedes me dicen

que yo hago el discurso del fiscal no yo

es que si existen conductas delictivas habrá que perseguirlas

ustedes siempre con cualquier motivo en cualquier ocasión y con cualquier pretexto

salvo que haya una sentencia que a ustedes les beneficie en el resto de los casos ponen siempre en solfa y aprovechan cualquier ocasión

entonces claro si hay una conducta delictiva ustedes qué proponen

que no actúen han llegado a decir no estaba aquí pero han llegado a combinar a la nueva consejera de seguridad

los piquetes informativos eso sí que campen a sus anchas que hagan lo que quieran que se comporten como quieran pero que la ertzaintza no actúe que los fiscales no actúen y que los jueces no actúen

vamos lo que le suele gustar no en todos los sitios claro en las instituciones de las que ustedes gobiernan pero en otros sitios la ley de la selva

simplemente decirle a la señora otadui que efectivamente los ingresos a la hora de elaborar un presupuesto son muy importantes pero hace un año cuando

lópez lehendakari entonces propuso

modificáramos eso también eran importantes los ingresos lo que ocurre que parece que los ingresos son importantes desde que ustedes gobiernan

de la reforma fiscal cosa que podíamos ya desde hace un año llevar trabajado

buenas tardes la propuesta que trae el grupo socialista tengo que reconocer que es una iniciativa

a la que trataré de responder puesto que en la misma no se contiene ningún elemento que haga

propuesta y de paso explicar al grupo parlamentario eh bildu las razones por las que he considerado que no teníamos muchas posibilidades de aproximación visto que del enunciado de su enmienda claramente se advierte que ellos no apuestan por el contenido fundamental de nuestra iniciativa y es que en la noveno legislatura la legislatura pasada el señor agirrezabala trajo como consecuencia de una interpelación una moción

planteando que el gobierno vasco apoyara la creación de un fondo de compensación

por enfermedades laborales derivadas del amianto había también otra petición que planteaba la elaboración de un plan vasco del amianto en el debate que se sustanció entonces se cruzaron dos enmiendas transaccionales una

que entonces estaba en el grupo mixto por eusko alkartasuna y el señor arana de ezker batua y otra

aquella transacción firmada por nuestro grupo y el grupo popular que fue finalmente la que prosperó planteaba efectivamente crear una ponencia para que se llevara a cabo trabajos de estudio y análisis sobre la eventual posibilidad de establecer o crear un fondo

y tratando por otra parte de formarse una opinión y un criterio más o menos formal lo que defendíamos entonces los socialistas lo defendemos hoy

no hemos cambiado de opinión por mor de que antes estuviéramos en el gobierno y hoy en la oposición

la constitución de aquella ponencia dio como resultado una primera impresión general y era la gran complejidad que tenía el asunto aunque se estableció un plazo para

concluir su tarea y tener sus conclusiones que era

estos trabajos no concluyeron precisamente por la densidad y el volumen

generando de la complejidad del tema da buena cuenta el dossier que está elaborado por la dirección de estudios de esta cámara en el cual se pueden analizar

toda la documentación atinente al tema que nos trae que realmente de su lectura si quiera superficial ya se deduce realmente que estamos ante un

no se somete a plazo porque realmente es difícil saber en qué momento pueden llevarse a cabo conclusiones esto sería en todo caso de constituirse dicha ponencia

el trabajo queda agotado en diferentes legislaturas

en este parlamento se han tratado cuestiones relativas al amianto en el congreso de los diputados

ninguna de las cuales se ha cumplido nosotros creemos que este parlamento que ha avanzado ya trabajos que ha mostrado una voluntad y que ha mostrado sensibilidad con los afectados por el amianto y la problemática que lleva asociada

y entendemos que sería un flaco servicio a la sociedad crear esas expectativas y que el parlamento finalmente terminara por no dar

que tiene sentido terminar con ellos y entendemos además que precisamente por la dificultad y por la complejidad que tiene el tema

no exento de dificultad porque realmente en aquella legislatura que los trabajos de la ponencia como digo fueron pues entre diciembre del dos mil once

en esos trabajos la ponencia realmente lo que tuvo es comparecencias presencias de afectados de expertos

su parecer y sus opiniones al respecto y ese era digamos el momento

de gestionar porque era escuchar ahora hay todo un volumen de documentación y de información que hay que digerir que hay que gestionar hay que analizar y de ahí hay que sacar las conclusiones y desde luego

que se me antoja realmente duro pero por eso eso lo hace especialmente atractivo y además creo que prestigia a esta cámara

que sea el gobierno vasco el que trabaje a favor nosotros seguimos creyendo entonces como ahora que esto es un trabajo que debe hacer el parlamento el parlamento vasco insta

a que se haga un plan con medidas concretas

que hoy por hoy las cuestiones relativas a la prevención contra los problemas derivados del amianto es una problemática que tiende a disminuir porque como deben de saber sus señorías el amianto está ya prohibido su fabricación y su comercialización

que son disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajos derivados del amianto donde se establecen los protocolos que deben de seguir las empresas autorizadas que trabajan con estos materiales y deben de seguir estrictamente esos protocolos por lo tanto la legislación es profusa y abundante sobre como debe operarse con ellos por lo tanto creemos que no añade nada nuevo

otra cuestión también recurrente que es la de instar a que se haga un mapa de las instalaciones que contienen amianto

porque se ha demostrado además que suponiendo que eso fuera factible que no lo es los costes de esa operación de mapear las instalaciones con amianto serían incalculables y según estudios que están realizados

inconvenientes que presenta que ventajas porque para poder hacer una detección de dónde se encuentra el amianto hay que llevar a cabo prácticas de mecánica que terminan por dispersar fibras con lo cual contribuyen a agravar el problema es verdad que se pueden hacer algunas cosas pero no me voy a detener hoy en ello aquí porque pienso que esto da mucho de sí y no

dice también la enmienda de bildu que insta a que los convenios de colaboración entre el instituto nacional de seguridad y salud y el gobierno vasco bueno

para todo lo que es la vigilancia ocupacional de los trabajadores que en su momento

al trabajo con amianto hay también un porcentaje muy alto de causas no laborales que tienen que ver con la contaminación ambiental esas causas también han dado lugar a un número importante también de afectados

hay información abundante sobre los mismos y no quiero aburrirles con ello por último decir que la razón de ser de todo esto tiene que ver con que hay una judialización abundantísima

que hace plantear diferentes problemas a la hora de demandar a una empresa que ya no existe por ejemplo porque hay que decir por si alguien no lo sabe que las enfermedades derivadas del amianto tienen entre otras peculiaridades el hecho de que tienen un periodo de latencia muy largo es decir puede haber manifestaciones de enfermedad

a los treinta o cuarenta años de haber estado expuesto por lo tanto el problema mayor no es tanto como digo las cuestiones preventivas como el hecho de que ahora afloran muchos casos de personas que en sus momentos estuvieron expuestas al amianto y que ahora

este tipo de fondos existen existen en europa en países como reino unido como alemania como suecia como francia como italia como bélgica por lo tanto estamos hablando de un fondo que otros países lo han establecido precisamente a efectos de evitar la judialización excesiva y a efectos de que nadie quede digamos

claro esos modelos son diferentes todos ellos parte del trabajo de esta ponencia consistirá en analizar realmente cuál sería el modelo que mejor se acomodaría

a nuestro ordenamiento y a partir de ahí sin poder avanzar lógicamente conclusiones porque esas serán las que surjan de la ponencia en caso de que así se apruebe pero en todo caso el contenido de las mismas tiene que estar enfocado precisamente a ver tiene un fondo de esta naturaleza y qué posibilidades y qué tipo de iniciativas desde este parlamento se pueden llevar a cabo eventualmente para

lo ha resumido muy bien la legislatura pasada los partidos políticos con representación en esta cámara

de crear un fondo de compensación dirigido a esas enfermas enfermos y sus familias y es lo que aquí se está solicitando mediante

no de ley nos alegra saber que hay cierta sintonía en este tema

de sorprenderme por el cambio de actitud del grupo socialista

señoras y señores del grupo socialista lo que ustedes están solicitando hoy aquí hace poco más de un año lo presentó efectivamente el señor agirrezabala hoy parlamentario de euskal herria bildu no lo apoyaron de verdad me alegro mucho por su cambio de actitud pero he de decirles que hemos perdido más de un año si en realidad

podían haberse acercado a tratar nuestra enmienda y a intentar

anunció en junio de dos mil once que el gobierno vasco estaba trabajando en la elaboración de ese plan

estamos en el mismo punto hoy a través de nuestra enmienda han vuelto a tener la oportunidad de aprobar la creación de ese plan

no no están de acuerdo porque como digo ni tan siquiera se han interesado en negociar nuestra enmienda por tanto antes no quisieron plan

todos sabemos que en ese registro de empresas son todas las que están pero no están todas las que son eusko

no se pueden quedar en la proposición no de ley del grupo socialista es interesante que fuesen un poco más allá gure taldearentzat funtsezkoa da

original estamos a favor de la creación de una ponencia sobre el amianto creo que durante la pasada legislatura esta ponencia hizo

y lo que se trata es de que continúen los trabajos realizados y finalmente cuanto antes se obtengan las mejores soluciones y los mejores resultados para

los afectados por este asunto del amianto nada más y muchas gracias

sí gracias señora presidenta la verdad es que no pensaba salir pero créame señora blanco

descortesía a todas las personas que durante la pasada legislatura hemos trabajado en la ponencia creo que el trabajo que se ha hecho es muy importante si ha tenido

hacer las propuestas que ha hecho sabiendo o creo que sabe

los fondos que existen son diversos y de muchos tipos y que no es tan fácil y que hacer un plan se lo ha dicho el señor itxaso

y a mí me parece que un grado de humildad le hubiera venido bien y que lo importante es que trabajemos que nos informemos y que trabajemos que continuemos el trabajo que se ha hecho en la legislatura anterior y que vayamos incorporando más conocimiento para poder tomar una iniciativa que de verdad

el amianto ha generado en parte de la sociedad yo le pido de verdad respeto por el trabajo que se ha hecho en esta cámara y creo que su intervención

arratsaldeon como ya ha comentado el señor itxaso por acuerdo de quince de diciembre de dos mil once se constituyó en el seno de la anterior comisión de políticas sociales

de este parlamento una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido los fines y las responsabilidades de un posible fondo de compensación por los problemas derivados del amianto se perseguía

que sus recomendaciones pudiesen incorporarse a la estrategia vasca de seguridad y salud laboral el desarrollo de esta ponencia durante dos mil doce

y paciente en el campo de las normas desde la inicial e incipiente normativa recogida en el decreto de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno

nocivas y peligrosas en la que se crea un libro de registro de empresas con riesgo de amianto pero no se establece medida de protección individual alguna

a este problema hasta la orden de siete de diciembre de dos mil uno a partir de ese momento quedó prohibida la utilización producción y comercialización de las fibras de amianto y de los productos que las contenían

en dos mil seis como también ha comentado el señor itxaso se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud hoy la única posibilidad teórica de exposición al amianto debe ser la manipulación de los materiales que se utilizaron con anterioridad al dos mil uno

es decir serían los trabajos de mantenimiento retirada desmantelamiento demolición transporte tratamiento y vertido de estos materiales en el campo del conocimiento de nuestra concreta realidad el uso del amianto en euskadi se inicia en grandes cantidades durante la década de los sesenta

hasta mediados de los setenta siguiendo unos parámetros de utilización similares a los europeos su manipulación se realizaba con total ignorancia de su nocividad por falta de información y de formación

mil novecientos ochenta y cuatro marcó un cambio con el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto se inicia la época del conocimiento de la nocividad

se crea el registro de empresas con riesgo de amianto rera y se fijan valores límites de exposición lo llamado concentración promedio permisible en la actualidad en la comunidad autónoma tenemos más de ciento cincuenta empresas registradas en el rera

la práctica totalidad de estas empresas se dedica a los trabajos vinculados

nos quedan efectivamente muchos productos con amianto que debemos retirar en los próximos años fundamentalmente diferentes modalidades de

tuberías bajantes y gran parte de este

está instalado en pequeñas construcciones particulares casetas garajes cobertizos depósitos muchos de ellos

en definitiva una cuestión multidisciplinar sanidad medio ambiente trabajo industria y agricultura en el campo de las posibles actuaciones

detalladamente el ámbito de la prevención de la exposición el ámbito de la vigilancia de la salud y el ámbito de la compensación y en este último sentido será necesario estudiar detenidamente los modelos existentes en otros países persiguiendo criterios de garantía de compensación a las víctimas

y economía procesal a pesar de todo lo avanzado los objetivos de todo lo avanzado con la ponencia los objetivos con los que esta nació los objetivos de estudio aquellos objetivos

conocer el estado de la ciencia médica en esta materia de las experiencias extranjeras

de la posición de la seguridad social y de las mutuas de trabajo de las demandas sindicales en relación al problema y sobre todo conocer la problemática revelada por los colectivos de afectados en orden a establecer un fondo de compensación para su protección no pueden considerarse objetivos del todo cumplidos

consideramos oportuno apoyar la proposición no de ley del grupo socialista en orden a recuperar las reflexiones realizadas en el seno

y darles continuidad en un órgano de trabajo equivalente dentro de la comisión de empleo política social y vivienda besterik ez eskerrik asko

señor maneiro señora lópez de ocariz señor aiartza muchas gracias por su apoyo

al grupo enmendante creo señora blanco que no me he debido explicar bien

todos estamos de acuerdo en que esto del fondo parece muy interesante pero nosotros hemos residenciado el trabajo de estudio y análisis sobre un eventual fondo aquí y he dicho a sabiendas de que es un trabajo ingente duro y áspero

entiendo que va a ser bastante farragoso ojalá ojalá este como otros muchos problemas se pudieran solucionar poniéndose una camiseta pero realmente este es un asunto que va a implicar esfuerzo dedicación y entrega y eso no significa que de aquí vaya a salir un fondo pero sí va a salir un criterio de este parlamento que esta es otra de las finalidades prestigiar esta cámara porque

pero hay cosas de impulso político que pueden hacerse aquí porque hay herramientas y hay útiles para poder llevar a cabo ese trabajo y porque ya se ha avanzado

un informe que hace osalan y efectivamente ese informe aquí tenemos un problema de nomenclatura porque a veces los informes los planes no se sabe muy bien

de sus partes dicho informe habla de la naturaleza de la actuación de los datos en temas de vigilancia postocupacional datos de la enfermedad historia

actividades de prevención de riesgos laborales conclusiones medidas preventivas recomendadas en fin en esos informes hay ya

que solamente habría que coger y poner en la carátula plan y posiblemente eso

estoy seguro de que no tendrían ustedes seguramente nada más que añadir porque ya se ha dicho también en este caso por parte del grupo nacionalista existe una legislación abundante precisa

no hay empresas que trabajan con amianto hay empresas que están autorizadas para los trabajos de desamiantado y en todo caso visto que

por ejemplo osalan podría formar perfectamente a los técnicos municipales porque es verdad que ahí hay una casuística que no está bien abordada

digamos previa de osalan sobre cómo actuar en todos los casos de obras que se hacen en el ámbito local pero de lo que estamos hablando aquí es de una ponencia

ingente para que sus propuestas tengan suficiente consistencia y solvencia dentro del contexto europeo esa es la razón de ser de esta propuesta insisto

en su día no votamos la propuesta que hizo el señor agirrezabala explicamos los motivos y hoy los hemos reiterado eso es todo

es cierto que usted también apoyó la creación de la ponencia la legislatura pasada pero también debo decirle que el texto que hoy aquí se ha presentado por parte de eh bildu se diferencia en muy poquito al texto que se presentó en la legislatura pasada y también lo aprobó entonces no entiendo muy bien tampoco

al partido popular no sé he oído que

respeto me debería informar si respeto a la ponencia tenemos nadie está diciendo que no tenga respeto a la ponencia que no tengamos respeto a la ponencia

hay que terminar con la ponencia para que luego esas conclusiones se puedan aplicar le diré que además de descortés y de faltar el respeto a la ponencia y no sé qué más soy también un poquito inteligente y

viendo y lo que le digo al partido socialista es cierto que no estamos no estamos en contra de esa ponencia pero

que no se ponga una fecha de finalización porque es que por lo que he podido ver en esa ponencia los mismos grupos que ayer participaron pedían medidas urgentes y concretas

mucho más y sí que creemos que alguien tiene que tomar medidas en esta ocasión nos toca al parlamento y también al gobierno besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko blanco andrea mixto upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza sí de manera muy breve otra vez y únicamente para responderle

de su propuesta que puede recoger planteamientos razonables lo que décimos es que ya

que trabajó mucho y bien aunque un servidor no participó en ella

y por lo tanto formó parte de esa ponencia pero me consta y nos consta que se realizó un buen trabajo y lo que hacemos nosotros es tratar de dar continuidad a esa ponencia para que siga

y efectivamente alcance los resultados óptimos que todos sin excepción espero deseamos puedan alcanzarse ese es nuestro deseo creo que hay mucho trabajo

de esas cuestiones que ustedes plantean y de muchas otras yo creo que el mejor camino posible es poner en marcha otra vez esa ponencia para continuar los buenos trabajos que efectivamente se han realizado hasta ahora esa es la explicación sencilla del voto favorable de upyd a la propuesta original gracias

ha presentado esta iniciativa para su debate en pleno en la que plantea la necesidad de que el gobierno vasco aborde el desarrollo normativo de una figura novedosa con una denominación también curiosa recogida en la ley vasca de emprendedores

privado un desarrollo normativo que prevé la ley que consideramos debe ser una prioridad para este ejecutivo

al servicio de los emprendedores a través de esta figura la financiación necesaria para continuar con su proyecto en este sentido la comisión europea ha manifestado en numerosas ocasiones

de la unión europea de afrontar con éxito los desafíos de la competitividad y del crecimiento depende sobre todo del dinamismo del espíritu

para la competitividad y el crecimiento de una economía la creación y transmisión de empresas la existencia de empresarios dispuestos a lanzarse

innovadores y el crecimiento de las empresas contribuye alcanzar

la realidad en relación con el emprendimiento en españa y en euskadi pese a los esfuerzos realizados es que estamos a años luz respecto a otros países como estados unidos y europeos como alemania dinamarca o suecia

para convertir su modelo de negocio en una realidad y tampoco tendrá apenas problemas en conseguir el capital necesario para hacer crecer su negocio si en estos países la lucha para obtener capital semilla es encarnizada por los numerosos proyectos

en españa lo es más aun pero por la escasez del mismo

la financiación necesaria esto nos lleva a señalar un problema que subyace y que es la llamada fuga de cerebros

a capital extranjero con lo que la posibilidad de que sus empresas acaben controladas por capital extranjero y cambien su domicilio fiscal aumenta considerablemente y en este contexto es en el que se sitúa esta iniciativa que presentamos la creación del capital semilla que opera en un momento decisivo del proyecto empresarial como medida de apoyo al emprendimiento y la creación de empleo desde el partido popular tenemos muy claro la necesidad

esta actividad y por ello el gobierno de españa busca el apoyo de la unión europea para que se destinen fondos europeos a la lucha contra el paro juvenil en nuestro país y para ello presentará un amplio paquete de medidas de apoyo a las pymes del que ya hemos conocido en los últimos días algunas medidas

base del modelo de formación dual al tiempo que los contratos a tiempo parcial se han incrementado en un veinticinco por ciento en dos mil doce se firmaron ochenta y dos mil doscientos treinta y ocho nuevos contratos de emprendedores de los que la mitad se han suscrito con jóvenes

que de otro modo tendrían muy complicado el acceso al mercado laboral señorías sin ánimo de parecer voluntarista

los datos nos indican que las medidas del gobierno de españa comienzan a dar sus frutos ya que tenemos

y muchos inversores extranjeros vuelven a confiar en los bonos y la deuda española españa gracias al esfuerzo de los ciudadanos ha cumplido con el objetivo de ingresos

imprescindible para financiar los servicios públicos y reducir el déficit euskadi en el ejercicio de sus competencias amplias por cierto en esta materia debe también sumarse a la puesta en marcha de iniciativas concretas a la espera de la aprobación del plan vasco de emprendimientos sobre el que debatimos la semana pasada no podemos arriesgarnos a que proyectos empresariales iniciados

puedan correr riesgo por ello consideramos que cuanto antes se deben poner medios como el que hoy planteamos a través

lo que significa es una nueva figura de financiación en este sentido hemos llegado a un acuerdo entre la iniciativa original y las enmiendas presentadas una vez más el escollo principal

de un reglamento no solo de un decreto

por la elaboración del mismo sino por también el procedimiento que tiene que pasar con los informes que necesita hasta su aprobación definitiva

por satisfechos con los términos de la enmienda de transacción ya que establece como plazo el recogido en la propia ley y si acudimos a la literalidad de la misma

de esta ley es decir con su publicación como se recoge

cuantos reglamentos sean precisos para su desarrollo y aplicación teniendo en cuenta que la publicación se produjo el seis de julio del año dos mil doce creemos

más que suficiente para poder trabajar y aprobar cuanto antes este decreto termino señorías agradeciendo a los grupos que firmamos la transacción su disponibilidad para llegar a este acuerdo y solicito

esta enmienda de transacción el apoyo a una iniciativa imprescindible en estos momentos muchísimas gracias

con el decíamos ayer de fray luis de león me remito a lo dicho la semana pasada sobre cómo interpretar la ley efectivamente hemos alcanzado un acuerdo pero no voy a

en la que planteábamos varias cuestiones referidas a las redes de inversores a los microcréditos

plantear en este caso la estructura de un decreto para el fondo del capital semilla nos parecía que un desarrollo así filetear

eso iba a plantear un desarrollo reglamentario disperso y entendíamos que era mejor un desarrollo reglamentario digamos único aunque eso implique más tiempo de elaboración

y de desarrollo y aplicación de la misma y no tenerlo de una forma fragmentaria y atomizada con diferentes decretos en función de las propuestas que fueran surgiendo en cada momento hacíamos hincapié en estas cuestiones de los microcréditos hablábamos de los avales

precisamente porque uno de los problemas que tiene ahora el día del mundo de la empresa y los emprendedores de nueva creación es precisamente

está en la financiación y todos los instrumentos de financiación que puedan habilitarse son precisamente

la falta de financiación es uno de los problemas existentes

pero permítame señora quiroga en fin sin ninguna impertinencia por mi parte decirle que yo no abundaría mucho en el discurso de las cosas que van tan bien y esas señales que parecen un cambio de ciclo yo sería un poco más prudente porque en este momento el parámetro el parámetro social por el que se guía toda la opinión pública

de quién esté gobernando es simplemente una sugerencia porque creo que no están

cantos de sirena a lo mejor es verdad pero eso solo lo sabe alguno que tenga bola de cristal porque los que se dicen economistas yo creo que poca credibilidad tienen a día de hoy sin más

para hacer algunos comentarios con respecto a las intervenciones de los diferentes portavoces en cuanto

la enmienda que usted me planteaba es recoger

recoger también esta ley de emprendedores y hacer con ello una enmienda y usted en este sentido me plantea que lo más razonable sería que el desarrollo de esa ley fuera único es decir con un único decreto que desarrollara todas esas figuras

es decir de este parlamento de esa ponencia que estuvo estudiando esa ley que estuvo desarrollando ese proyecto de ley fue la de establecer que

específico en un decreto por eso hemos traído esta iniciativa por eso pedimos que se desarrolle este decreto

si igual podían haber dicho que todas las figuras que recoge de emprendimiento ese proyecto de

desarrolladas en un solo decreto el caso es que la voluntad del legislador ha sido esta

para cumplirse mi experiencia en este parlamento y sobre todo despúes de ver las leyes que se han aprobado en este parlamento muchas veces lo que más le cuesta a una ley no es que no sea buena

se suele decir al cabo de cinco o seis años esta ley que se ha aprobado sobre esta materia no ha tenido efecto y cuando uno repasa se da cuenta que es que lo que ha pasado es que no ha tenido desarrollo por tanto no podemos saber si ha sido buena o mala es que no se ha desarrollado

en un momento en el que tenemos que apostar ahora por el emprendimiento

desde el grupo popular consideramos que no podemos permitirnos el lujo de estar aquí años

a desarrollar figuras importantes como estas que pueden mantener empresas que están naciendo ahora mismo por tanto nos parece que es el momento de ser exigentes y de ser exigentes con el gobierno vasco para que cuanto desarrolle este decreto y podamos contar con una figura y los emprendedores puedan contar con una figura de estas características que como les decía es una fórmula nueva de financiación y mire otra cosa yo he dicho que no quería

de confundir los deseos con la realidad nosotros somos muy conscientes de cuál es la realidad pero he venido con datos porque creo que también hay que poner en valor los datos positivos que se van produciendo estamos nosotros

creo que una de las cosas que está prohibida es hablar de los brotes verdes porque vemos que no llevan a ninguna parte preferimos venir con datos como los que yo he venido en los que ya se empieza a apuntalar datos positivos aunque sabemos que el gran reto es la creación de empleo

el representante de eh bildu yo después de escucharle a usted pues no sé si yo fuera un parado ahora mismo pues no sé cogería las maletas y emigraría porque

es que en un momento como el que estamos pues nos ha caído esta desgracia y no nos dan ninguna alternativa no nos dan nada

volver a los caseríos y volver al campo para tener un empleo o si no no entiendo porque ustedes qué nos plantean qué creen que vamos a salir de la crisis porque vayan a venir

es que salir de la crisis en este momento va a ser la creación de pequeñas y medianas empresas

empleando a personas esa va a ser la realidad por lo tanto una vez más su discurso como en otras cosas están fuera de la realidad por tanto nos parece que es importante apostar en este momento de dificultad en este momento

están ahí que necesitan esa financiación y que debe ser desde las administraciones desde las que reciban ese impulso para de verdad crear empleo
y salir de esta crisis muchísimas gracias eskerrik asko quiroga anderea euskal sozialistak taldearen

ya le he rogado disculpas por el atrevimiento pero explicarle que cuando el gobierno socialista presidido por aquel hombre tan terrible que

alguien de su gabinete habló de esa posibilidad le calló la del pulpo por eso mismo en base a la experiencia es por lo que le he dicho todo esto

en la que se trató esta ley yo no estaba y como seguramente sabe tampoco es posible acceder a ningún archivo videográfico porque las ponencias

desconocía ese dato sin embargo lo que sí conozco es que

en cuanto al decreto de estructura para el capital semilla y a las otras figuras digamos de fuentes de financiación también empleábamos tres meses porque entendemos nosotros también

de llevar a cabo cuanto antes en este caso un desarrollo reglamentario para poner en marcha ese instrumento

las decisiones y la acción política somos muy conscientes de eso y por esa razón poníamos unos plazos igual que usted como proponente

en que los plazos de ejecución sean los que la disposición final primera plantea

digamos controversias que sea las determinaciones de la propia ley las que establezcan el plazo

digo generosa porque yo hace no mucho tiempo en esta misma tribuna tenía que pugnar

y entonces me llama mucho la atención cómo en función de las témporas los plazos de exigencia van variando era eso lo que me llamaba la atención nada más

en la actualidad no solo no han mejorado las condiciones de vida del pueblo saharaui sino que estas

que vive europa y el conjunto de países que prestan su apoyo humanitario y cooperan con los refugiados persisten por parte del régimen marroquí el acoso policial y las vulneraciones de derechos civiles en los territorios ocupados del sahara occidental

un juicio sin las mínimas garantías contra el grupo de veinticuatro de

saharauis detenidos tras el brutal desalojo y desmantelamiento del campamento

anima a la ciudadanía y a las instituciones a apoyar y a cooperar desde el ámbito político y humanitario con el pueblo saharaui y a denunciar la situación de olvido y desamparo en la que se encuentra agravada

seis reitera su reconocimiento al legítimo gobierno de la república árabe saharaui democrática y su apoyo a los miembros del frente polisario

a sus representantes en la comunidad autónoma vasca y junto con las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui se compromete a mantener el papel de fiel aliado de la causa

siete se compromete a mantener a través del intergrupo parlamentario

y a través de la comisión de derechos humanos las actividades de solidaridad